eta baita unión progreso y democracia partiduarekin

datorren urteko ekitaldi ekonomikoan quería decir también segundo elemento importante dentro de este análisis del contexto macroeconómico que la economía vasca ha tocado fondo la economía vasca se encuentra estabilizada después de unos decrecimientos negativos este año inicialmente del cero coma cinco del cero coma uno y

en el tercer trimestre del año dos mil trece si vemos la evolución interanual también el freno del deterioro ha sido progresivo del uno coma nueve hemos pasado al uno coma cinco y del uno coma cinco hemos pasado

de caída de la actividad económica también en el empleo ha sido

y en este momento lo que analizamos desde el gobierno y el gobierno considera que el año dos mil trece vamos a terminar con una caída aproximada del producto interior bruto del uno coma uno por ciento también

una destrucción de empleo pero para el año dos mil catorce nosotros vemos unas posibilidades vemos unas esperanzas la economía vasca va a empezar a crecer

pero va a ser un crecimiento débil va a ser un crecimiento modesto

para el año dos mil catorce y va a ser un crecimiento que con esos estándares no va a ser suficiente para generar empleo neto el año dos mil catorce esta es la realidad en la que nos encontramos y este es el análisis que saben sus señorías que

cuando compareció ante esta cámara hace escasamente un mes para presentar los presupuestos y por lo tanto como

sigue siendo el mismo con los datos y las previsiones que tenemos para el año dos mil catorce hay otro segundo aspecto que creo que es importante tratar que es el contexto económico financiero

se insertan estos presupuestos es aquel en el que en este momento

de la recaudación para el año dos mil trece de un cinco por ciento con datos reales de las tres haciendas forales

por qué porque muchos ayuntamientos las tres diputaciones el gobierno vasco a lo largo de los últimos cuatro años han experimentado han sufrido el

no podían cumplirse desde el punto de vista de los ingresos y los derechos reconocidos debido

económica en la que nos encontramos eso da una tranquilidad da una seguridad para el cierre de las cuentas de todas las instituciones de los doscientos cincuenta y uno ayuntamientos las tres diputaciones

la prestación del setenta por ciento de los recursos derivados del conjunto de la recaudación vemos también para el año dos mil catorce

varias veces saben sus señorías que las cuatro instituciones que estamos presentes en el consejo vasco de finanzas acordamos y analizamos de común acuerdo que

que supondrán un incremento de la misma de un cuatro coma dos por ciento ese es un análisis que nos ha llevado también por los efectos que tiene la valoración del cupo a que mientras la recaudación y las aportaciones van a subir la recaudación un cuatro coma dos por ciento y las aportaciones

también por el efecto del cupo que hemos valorado en el conjunto de las cuatro instituciones

también quería indicarles que tenemos una serie de elementos importantes en el aspecto económico financiero en primer lugar tenemos un objetivo de déficit

que tenemos en este momento en el año dos mil trece y también inferior al que teníamos el año dos mil doce y por lo tanto eso tiene unas consecuencias económico financieras

algunos años en llegar a los volúmenes presupuestarios del año dos mil doce porque ya no tenemos como tuvimos el año dos mil doce unos ingresos extraordinarios y atípicos extraordinarios aquellos que correspondían a las desinversiones derivadas

que el gobierno realizó en naturgas y que supusieron ciento cuarenta millónes también unos ingresos atípicos que hubo también

como era la presupuestación inicial de una recuperación por ciento cuarenta millónes de créditos fiscales que se habían concedido en años anteriores y que en ejecución

en el presupuesto del año dos mil doce ya tenemos trescientos millónes de diferencia juntamente con ello el objetivo de déficit son tres décimas menos y como cuarto elemento que afecta al ámbito financiero es que el producto interior bruto desgraciadamente los últimos años de esta

depresión que estamos teniendo después de ocho trimestres consecutivos de caída intertrimestral pues también se ha reducido por tanto eso va a tener unas consecuencias financieras y tiene unas consecuencias financieras

se inserta y en los cuales se articula en este momento la economía vasca nosotros tenemos

bastante más elevado que la media de la unión europea españa está en la media de la unión europea nosotros tenemos treinta y siete puntos por encima

para el conjunto de la comunidad autónoma tenemos también en este momento

en ciencia tecnología e innovación en investigación nos ha llevado a que estemos una décima más por encima de la media de la unión europea lo cual es un indicador positivo en el esfuerzo de las empresas pequeñas y medianas empresas que han realizado en este país

en inversión derivado o destinado

del esfuerzo de los poderes públicos en los que el gasto se reparte entre un sesenta por ciento de las empresas y un cuarenta los poderes públicos en materia de investigación ciencia y tecnología

una décima por encima de la media de la unión europea y estamos bien en un elemento muy importante para nuestro tejido económico como es la productividad tenemos

pero tenemos también mejoras que obtener y dónde están los retos tenemos que mejorar

por los índices de productividad que nos hacen que si mejoráramos en la tasa de ocupación esas mejoras en la tasa de ocupación conllevarían

que daría también un apoyo y un mayor aporte al producto interior bruto del país

mejorar en tasa de ocupación y reflejo de ello es si analizamos desde el lado

una demanda externa bien estructurada con un saldo comercial positivo estamos manteniendo nuestro saldo de exportaciones

en toda la década anterior tanto antes de la crisis

el saldo externo nuestro es favorable incluso añadido el saldo energético por tanto tenemos

tasa de ocupación porque la mejora en tasa de ocupación nos va hacer que con esa productividad

del producto interior bruto va originar una creación de empleo no hay mejor política social que aquella que origina creación de empleo neto este es son elementos importantes que tenemos que tener en cuenta ante eso qué y entro en el cuarto aspecto de la intervención ante eso hemos presentado unos presupuestos que tienen como eje central el compromiso con las personas pertsonak dira

un compromiso con las personas y un modelo de desarrollo sostenible qué es un modelo de desarrollo sostenible un modelo de desarrollo sostenible es aquel que conjuga

que son tener un desarrollo basado en el conocimiento

basado en la cohesión o integración social y un desarrollo basado en la sostenibilidad tanto financiera como ambiental esos son los elementos los que nosotros hemos articulado en los presupuestos para el año dos mil catorce les decía a sus señorías que después de

con el grupo parlamentario socialista suscribimos un acuerdo

luego colaboró y se integró también el partido popular que forma parte también de ese acuerdo modificación de nuestras normas fiscales pero también desde el lado del gasto teníamos un acuerdo con el partido socialista de euskadi en materia de reactivación económica para los años dos mil catorce al año dos mil dieciséis con un conjunto de medidas de política económica y conjunto de medidas dirigidas

ensamblado y hemos participado y hemos coincidido en desarrollar políticas dirigidas a la mejora de nuestro tejido económico al emprendizaje

a la modernización a la economía social y hemos coparticipado y hemos coincidido en que en esta situación de crisis es bueno que haya unos presupuestos y desde las diferencias políticas que nosotros tengamos con el partido socialista de euskadi o con el

hay también un compromiso para ayudar a salir de la crisis con el partido unión progreso y democracia hemos tenido

dentro del juego político es lícito que desde su prisma político mantenga su personalidad con euskal herria bildu también

pero mantenemos discrepancias también políticas que euskal herria bildu nos hizo llegar también

documento al respecto donde no coincidían con el proyecto de presupuestos

pero el gobierno ha presentado con ese prisma el proyecto de presupuestos

primer lugar como les decía al desarrollo económico y

qué emprendemos emprendemos una serie de vectores en primer lugar la reactivación del empleo qué es la reactivación del empleo la reactivación del empleo es un conjunto de medidas dirigidas a estimular la creación de empleo en el ámbito

la inserción socio laboral de personas menos desfavorecidas la apuesta por el aprendizaje por el emprendizaje y la apuesta por mejorar la situación

respecto al programa que está vigente el año dos mil trece y

semanas será presentado por mi compañero señor aburto ante todos ustedes ante la opinión pública en segundo lugar mejoramos la inversión en el desarrollo económico

de eso importante el esfuerzo inversor que hacemos de cincuenta y siete millónes de mejora en nuestra red interna de ferrocarriles donde la red tranviaria nuestra

es un elemento importantísimo donde el esfuerzo inversor que va a prestar la mejora de toda nuestra red interna de ferrocarriles juntamente con el sostenimiento

que se mantienen en treinta millónes de euros tenemos un esfuerzo muy importante en materia de investigación de desarrollo e innovación qué hacemos al respecto destinamos doscientos diez millónes en este ámbito

las medidas de tecnología tenemos en este momento un compromiso que es abordar un esfuerzo importante de modernización del país en el que como decía anteriormente

en el capital humano en el capital de las personas en la preparación en la formación y además de la educación la investigación la innovación son elementos cruciales son elementos nucleares apostamos por una estrategia de especialización inteligente dentro de los programas

de la unión europea ahí hemos hecho un esfuerzo importante dentro de la modestia que tenemos todavía con los recursos

comparado con años pasados donde tenemos que hacer frente a crecientes demandas de necesidades con una estrechez de recursos económicos estamos

ese punto intermedio entre mejorar el capital humano pero con también con unas dificultades en cuanto a los recursos económicos tenemos por otro lado diecisiete millónes destinados a la mejora en la investigación

treinta y siete millónes también que mejoramos algo dos puntos en materia de política científica

treinta y seis millónes en materia del fondo innovación donde se mejora también

biosanitaria un conjunto de recursos que conforman un esfuerzo inversor importante de doscientos diez millónes en nuestra estrategia de

materia de desarrollo económico el presupuesto pone hincapié también en el ámbito relativo a los proyectos estratégicos

al emprendizaje a la internacionalización a este primer área destinamos sesenta y nueve millónes

veintidós millónes en conjunto son ciento dos millónes

he indicado en materia de tecnología envolviendo

a la política de inversión en materia de gasto público la política financiera sirve de instrumento

política financiera disponemos de herramientas para poder tener en nuestro tejido económico mecanismo de financiación del circulante de las pequeñas y medianas empresas autónomos profesionales independientes tener un programa

en virtud del cual pequeñas y medianas empresas pueden hacer un esfuerzo de inversión en proyectos que sean importantes tenemos líneas con las sociedades de garantía recíproca además de financiación ordinaria de inversión

una política de microcréditos a través de nuestras herramientas financieras

como gobierno en fin la envolvente financiera coadyuva al conjunto de las políticas de gasto de política económica destinamos

del turismo veinticinco millónes a la mejora del comercio en fin este conjunto de medidas que también

con ciento nueve millónes destinados al sector primario suponen un esfuerzo importantísimo

por lo tanto esta es una de las patas del modelo desarrollo sostenible un desarrollo económico basado en el conocimiento

y por lo tanto un crecimiento armonizado un crecimiento sostenido y un crecimiento

quería hacer referencia también a otro lector que es el relativo al crecimiento sostenible crecimiento sostenible donde la estrategia del gobierno pasa por el cumplimiento

una reducción del veinte por ciento en la emisión de gases de efecto invernadero un aumento de la eficiencia

y un aumento en el consumo de las energías renovables otro veinte por ciento destinamos casi veintiséis millónes a la protección ambiental
isiltasuna mesedez destinamos también esfuerzos importantes dentro del conjunto de presupuestos del ente vasco de energía

a la sostenibilidad y al esfuerzo en políticas de ahorro energético y de ahorro dirigido también a través de planes de estimulación de la demanda a través de mejoras en nuestro sistema de eficiencia energética sobre todo también a impulsar

renovables la sostenibilidad financiera también es un elemento importante tenemos que dejar a las siguientes generaciones que puedan disponer de los recursos económicos por su leal saber y entender dejar unas cuentas y unas finanzas públicas que les permiten hacer las políticas públicas que ellos consideren oportunas

y abordo otro área que considero muy importante dentro del conjunto del presupuesto que es el relativo al crecimiento

los presupuestos ponen el énfasis como les decía señorías en dos elementos en

en la protección del modelo vasco de protección social hemos analizado los esfuerzos y los hincapiés que la política económica del gobierno en su área presupuestaria

al área de desarrollo económico en el área del modelo vasco de protección social tengo que señalar señorías que tenemos un esfuerzo importante en lo que es nuestro sistema sanitario tres mil trescientos cincuenta y uno millónes se destinan

doscientos quince millónes un treinta y tres por ciento del mismo al sostenimiento y a la mejora del sistema de salud de los cuales fundamentalmente el setenta y cinco por ciento un ochenta por ciento es el servicio vasco de salud

juntamente con un contrato de programa que está complementado con un capítulo de inversiones

lo cual es un esfuerzo inversor importante los vascos tenemos en este momento un gasto per cápita sanitario

por lo tanto el eje de nuestro sistema sanitario es la mejora de las salud de las personas

en darles un estándar y unos servicios

de su salud y a la protección de la salud con un esfuerzo especial en materia de cronicidad porque saben sus señorías que tenemos un envejecimiento y como se habla también en ámbito social el envejecimiento del envejecimiento que a su vez es todavía

social muy importante tenemos un esfuerzo

el capital humano la inversión en personas es el elemento crucial para la mejora y para el futuro de nuestro país esa es la apuesta del gobierno la inversión en personas dos mil doscientos cuarenta millónes sino que es educación estricto sensu no el área de cultura

a lo que va desde la escuela infantil hasta el bachillerato pasando por la secundaria la formación profesional y la enseñanza y trescientos millónes a nuestro sistema universitario de los cuales

a euskal herriko unibertsitatea la universidad pública del país vasco tenemos también en materia de gasto per cápita por alumno

euros de gasto por alumno cuentas consolidadas año dos mil doce

sector de mantener y conservar

salud y educación que juntamente con el área relativo a la lucha contra la exclusión social conforman el setenta por ciento del gasto del presupuesto

cumpliendo los vascos tenemos también unos estándares de protección social muy elevado señorías llegamos a un gasto

el más elevado del estado es setecientos noventa y seis por habitante prácticamente casi duplicamos a la segunda comunidad autónoma en materia de renta de garantía sistema renta de garantía es un sistema en virtud del cual

recursos económicos que otorgan en este ámbito unos estándares de cohesión social y supone una transferencia de renta

es lo que está dando cohesión importante en un momento de crisis económica profunda por lo tanto la apuesta del gobierno

dentro de este ámbito de la defensa de nuestro modelo vasco de protección social donde se configuran dos elementos el derecho a tener una asistencia personalizada para la activación laboral e inclusión social y el derecho a tener unas rentas

bien por una retribución mensual para qué para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia de nuestros ciudadanos ese es el modelo del que nos hemos dotado los vascos y por lo tanto

en mantener la protección de nuestro sistema vasco de protección

a la ayuda a la familia al nacimiento por hijos a la conciliación de la vida laboral y familiar y también con servicios de acción directa como pueden ser la teleasistencia o los servicios de mediación familiar todo ese conjunto de elementos

al que va dirigido el presupuesto al que va dirigido el esfuerzo inversor del gobierno todo ello con un objetivo fundamental

nuestra economía mejorar y reactivar nuestro tejido económico crear empleo y mientras tanto hacer políticas de redistribución de cohesión social que nos permitan proteger a nuestros ciudadanos a nuestras familias en esta situación

nuevamente haciendo una reflexión a que como iniciaba inicialmente

estamos en un momento económico todavía de una profunda crisis pero

de salida de la crisis aunque esta vaya a ser modesta y lenta

esos indicadores nos han llevado también a hacer un presupuesto que va a ser importante para ayudar a nuestro tejido económico a salir de la crisis a reactivarlo bien mediante medidas

juntamente con ello como decía las medidas de protección social ha habido también un clima político distinto de cuando nosotros presentamos el presupuesto en marzo ha habido un clima de mejora juntamente con el acuerdo

el partido socialista de euskadi para la reactivación económica y para el empleo

que nosotros hemos cumplido y donde hemos hecho un esfuerzo importante y también hemos participado en un análisis sobre la mejora de nuestros autónomos los profesionales pequeñas y medianas empresas con el partido popular en ese contexto es como hemos

que creemos que van a ayudar a salir de la crisis pero salir de la crisis no es solamente salir de la recesión porque de la recesión podemos salir con dos trimestres consecutivos de crecimiento salir de la crisis es un concepto económicamente y

más amplio y por lo tanto los vascos vamos a seguir en una situación de crisis aunque salgamos de la recesión pero se han vislumbrado elementos muy importantes

y este conjunto de medidas que se articulan a lo largo de los

como elemento esencial para nuestros crecimiento económico en el año dos mil catorce nada más y muchas gracias eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna

bilatzen dugulako no es una enmienda para decir que no es una enmienda para proponer y construir y esta es la verdadera y última razón que nos ha llevado a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos presentado

una enmienda por tanto con un profundo cariz constructivo

una nueva realidad y lo queremos hacer aquí y ahora con unos instrumentos tan potentes como son los presupuestos de un gobierno

instrumentos más potentes para hacer política pero la verdad es que no vemos en este gobierno una actitud activa para romper con la idea conservadora de no se puede hacer nada esto es lo que hay y con la cual el liberalismo sabemos que intenta anular todo intento de cambio

en la apatía en la frustración en la sumisión a los que sufren esta situación de una manera injusta

son desigualdades inequidad falta de futuro y la desestructuración social el proyecto de presupuestos no da respuesta a las necesidades urgentes de la gente y por el contrario lo que hace es pedir más

a la ciudadanía este proyecto está más preocupado por no salirse de la línea marcada por el gobierno español que esas personas

que se dirigen a nuestro grupo para decirnos que les protejamos que les ayudemos

están dirigiendo la economía que hagamos algo ante quienes les niegan el futuro arruinan los sueños de los jóvenes

los proyectos de vida de tantos miles de personas porque este proyecto no da respuesta a más de

es más reconoce que en el dos mil catorce va haber cuatro mil personas más paradas

el cierre de fagor y de edesa y de aquellas empresas subsidiarias que dependen de esas empresas

solo piensa levantar acta de la gravedad de esta situación una buena medida por ejemplo hablando de creación de empleo

y es un ejercicio que se está haciendo diariamente cada vez que se amplía la jornada laboral

desde el primer día de las bajas se está destruyendo empleo aurrekontu hau ez da aurrekontu soziala babes sozialaz mintzatzen da

cuando vemos que de los seiscientos millónes menos que tiene este presupuesto respecto al anterior trescientos treinta y tres van a sustraerse de educación

a mantener los mínimos si renuncia a ingresar más implantando una fiscalidad progresiva

realmente en un ciento veintitrés coma cuatro por ciento es

con un monto total de setecientos noventa y dos millónes de euros creemos que realmente sí tenemos capacidad para un endeudamiento tenemos un pib de más de sesenta y seis mil

euros tenemos capacidad pero así como décimos esto también décimos

con el estado en la comisión mixta del concierto una revisión de la deuda y hasta qué punto la deuda es legítima o es ilegítima y cuáles son y en base a qué conceptos se va a negociar esa deuda

un aspecto clave en general para las mujeres porque sufren

los recortes sociales en primer lugar salen perjudicadas porque son la mayoría entre el personal

por otra parte sufren el recorte y la pérdida de calidad como usuarias que son de estos servicios y en tercer lugar son las mujeres las que se encargarán de suplir los servicios públicos que no se presten porque serán ellas y sobre todo ellas

de las personas que necesitan cuidados y los jóvenes tampoco tienen un panorama mejor están en la edad de emprender una vida autónoma y la disyuntiva que se les plantea es

donde van a hacer contratos de trabajo por semanas por días e incluso por horas qué les hemos contado y qué les vamos a decir qué les vamos a dejar van a poder construir una euskal herria esa euskal herria que tenemos en mente cuando no puede ni siquiera construir un hogar propio

a estos jóvenes que les hemos formado y que les estamos formando y que les estamos transmitiendo una lengua

que no podemos esperar a una normalización económica para darle más medios y más atención porque igual cuando salgamos de la recuperación económica

la austeridad no es la única solución ni la mejor para épocas de crisis

los que siguen ganando ahora y los que pretenden seguir ganando después

la apuesta por el tav no es solo un error por su falta de viabilidad por la nula rentabilidad social y por el gravísimo e irreparable impacto ambiental no es solo una sinrazón por su dificultad para el mantenimiento y por lo incierto de su conexión es además

por un modelo de desarrollo económico que no resuelve los problemas que nos preocupan el negocio del cemento no genera valor añadido devasta

el dinero común para satisfacción de constructores y quizás para satisfacción del ego de algún político madrid decide la ley de estabilidad presupuestaria y todos a cumplirla sin rechistar

un documento con el partido popular vasco donde se compromete acatar lo que hasta ahora no había querido explicitar

ni siquiera en su propio programa electoral y dice y cito elaborar una nueva ley de régimen presupuestario con el fin de introducir en la normativa presupuestaria los principios de estabilidad presupuestaria

y plurianualidad así como adecuar y acomodar el procedimiento presupuestario a la regulación reglamentaria de la unión europea argiago ezin da esan

lan horretan jarduteko tenemos que transitar hacia otras prioridades y poner el foco en la consecución de una sociedad más justa

apostamos en segundo lugar por un carácter estratégico del primer sector

aportar una cantidad de cinco millónes de euros precisamente para promover la introducción de los productos autóctonos en los comedores escolares porque es una manera más y eficaz de proteger a los productores vascos y de tener un agro vivo

euro jartzea bosgarrenez sostengamos los servicios públicos y la protección social efectiva nos tenemos que dotar de recursos y por lo menos a las aes hay que aumentarles la cobertura mínimo en dos coma cinco millónes de euros más

para garantizar la dignidad de la ciudadanía y en especial la situación laboral y social de las mujeres y para ello proponemos en general un aumento del cinco por ciento de los sueldos de los trabajadores públicos en cuatro años un cinco por ciento cada año para poder llegar a equiparar el veinte por ciento de pérdida

y esto lo cuantificamos en ciento cuarenta y ocho millónes de euros anualmente en lo que se refiere a la enseñanza creemos que hay que aumentar las partidas en cuatro temas estratégicos

elaborar la ley del sistema público vasco cinco millónes para crear ayudas para los estudiantes vascos multilingües trece millónes para el currículum vasco

como espacios naturales que son de la actividad económica y del desarrollo y por eso queremos apostar

un páramo demográfico económico y social donde solo estén enclavadas

firme por el reparto del empleo una sociedad equilibrada

y dentro del equilibrio del empleo hay que mencionar las políticas de igualdad para las que dedicaríamos diez millónes de euros especialmente para hacer un plan de coeducación porque pensamos que es fundamental para el futuro

beste bost milioi gehiago como se puede ver venimos a este debate con crítica y con propuesta

hacia dónde nos lleva la aceptación acrítica del actual modelo socioeconómico que hace el partido nacionalista vasco

incondicionalmente por otros dos partidos y lo hacemos de una manera crítica porque precisamente crítica es la situación de la ciudadanía pero con propuesta

otra posibilidad que un gobierno puede y debe hacer más que gestionar la miseria que es posible iniciar

que sí se puede que las instituciones y que los gobiernos sirven para algo eta proposamena egiten dugu gu

esaten denean la responsabilidad financiera y presupuestaria exige continuar con la senda marcada por el plan económico financiero con el objetivo de mantener las cuentas públicas bajo control y poder cumplir los objetivos marcados por la unión europea para el dos mil veinte norma foral

esaten denean la elaboración y aprobación y ejecución de los presupuestos se realizará en el marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera coherente con la normativa europea y conforme con lo establecido por le ley orgánica

y cuando se hablan de los objetivos de la estabilidad

destino de ingresos superiores a lo previsto los ingresos no finalistas que se obtengan por encima de lo previsto no podrán financiar nuevos gastos y se deberán destinar íntegramente a reducir la deuda viva o a evitar nuevas operaciones de endeudamiento

este se destinará a reducir la deuda viva o a evitar nuevas operaciones de endeudamiento

es decir que crecimiento no es sinónimo de desarrollo porque se puede crecer pero seguir no desarrollar las personas que están en una situación a las cuales

un trabajo me parece de una gravedad absoluta comparar el crecimiento con el desarrollo y pensar

estamos en una situación de salida de crisis el que va a tocar fondo es el que va a perder su piso o el que no va a conseguir trabajo en los próximos meses esa es la situación que se va a encontrar

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señores

lehendakari vamos a ver si soy capaz de explicar cuáles son las razones concretas por las cuales upyd presenta esta enmienda a la totalidad creo que de la lectura de esta enmienda a la totalidad y observando también qué es lo que ha dicho y hecho upyd en este parlamento durante los últimos años creo que

las razones que nosotros exponemos creo que se entienden perfectamente cuáles son las propuestas que nosotros planteamos cuáles son las exigencias que a este gobierno hacemos y cuáles son nuestras prioridades también en materia no solamente política sino en materia presupuestaria creo ya digo se entiende perfectamente bien vista la trayectoria de upyd nosotros no planteamos ilegalidades de ningún tipo lo que sí proponemos

para modernizar internamente euskadi y enfrentar de mejor manera

son unas prioridades distintas a las que tiene este gobierno

el partido nacionalista vasco y los partidos políticos que finalmente van a apoyar este proyecto de presupuestos comencemos definiendo este

de presupuestos en nuestra opinión es un proyecto de presupuestos de los partidos viejos y para los partidos viejos fundamentalmente elaborados o pactados para defender sus intereses partidario o blindar sus ámbitos de poder

las necesidades reales y los intereses generales de los ciudadanos vascos aurrekontu hauek alderdi zaharren eta alderdi zaharrentzako aurrekontuak dira

presupuestos y por ello es normal también que vayan a votar contra la devolución

que en algún caso también sino sobre todo porque se han quedado sin ideas

han renunciado a las que supuestamente tenían han renunciado

en este parlamento nosotros no nosotros mantenemos

que hemos defendido desde un principio este proyecto no nos engañemos demasiado es un proyecto continuista respecto a lo que se ha venido haciendo en el pasado profundamente conservador muy poco ambicioso y que consolida tanto los recortes sociales

como el modelo institucional vasco que nosotros queremos cambiar si observamos los presupuestos lo cierto es que están

las mismas partidas identitarias y las mismas o parecidas prioridades

también conviene recordarlo ya votamos contra los presupuestos de dos mil once y de dos mil doce y ya presentamos una enmienda de totalidad a los de dos mil trece

añade recortes y ajustes respecto a los últimos presupuestos aprobados de dos mil doce es un proyecto que no apuesta suficientemente

la ciencia las becas los centros tecnológicos las investigaciones estratégicas el empleo

y poner la base de un futuro económico mejora para todos para qué

principalmente a esos ciento setenta y cuatro mil setecientos desempleados vascos y poder superar

este proyecto no fortalece la protección social no impulsa suficientemente la actividad económica consolida un entramado institucional que upyd pretende cambiar

sustenta evidentemente un proyecto político nacionalista que nosotros no compartimos en absoluto por todo esto y más cosa que iré explicando nosotros pedimos a este parlamento que pida la devolución al gobierno de este proyecto

este proyecto es la base de una línea política que no compartimos porque no acompaña sino que sigue obviando las reformas modernizadoras que euskadi necesita este es un proyecto de presupuestos condicionado negativamente y lastrado por el entramado institucional vasco que los partidos políticos se niegan

este es un proyecto de presupuestos condicionado negativamente y lastrado por una administración paralela elefantiásica que el gobierno vasco se niega a reducir

y lastrado por una reforma fiscal poco ambiciosa y pactada en todo caso demasiado tarde y este es un proyecto de presupuesto condicionado negativamente y lastrado por una lucha contra el fraude fiscal

utzi nahiago du conviene recordar y tener presente que las actuales estrecheces presupuestarias o la situación

no han venido del cielo sino que son consecuencia de decisiones políticas tomadas en el pasado

que no se tomaron decisiones que correspondían haber tomado en muchos casos a este gobierno

instituciones vascas del mismo modo las futuras disposiciones presupuestarias o la situación económica del futuro dependerán de las decisiones que ya se hayan tomado o se decidan ahora tomar nosotros queremos insistir nuevamente en ello en que debieron de impulsarse

necesitaba y puesto que ahora siguen sin impulsarse muchas de ellas

ahora obviamente porque además tienen todas ellas repercusiones presupuestarias más que evidentes todas las reformas políticas y económicas que nosotros planteamos

tienen lógicamente repercusiones presupuestarias y por lo tanto es interesante y fundamental señalarlas en el debate de hoy así

para hacerlo más justo y progresivo lo cual nos habría permitido disponer para el ejercicio dos mil catorce de más recursos económicos que hubieran podido ser destinados a cubrir mejor las necesidades de la sociedad recientemente se haya impulsado una reforma del sistema tributario se hizo demasiado tarde por simple desidia política o por intereses de partido como siempre y además no tuvo necesario ni siquiera podemos afirmar que dicha reforma vaya a poder ser aplicada finalmente del mismo modo en los tres territorios históricos en ese sentido

en las juntas generales de los territorios históricos sigue siendo un obstáculo evidente para alcanzar más igualdad y la mejor política fiscal posible

residan en las juntas generales de los territorios históricos es contradictorio con que se defienda la armonización fiscal si es necesario armonizar para qué queremos tres haciendas o tres políticas fiscales distintas

está planteando que es necesario armonizar si hace falta armonizar para qué queremos

juntas generales de los territorios históricos si las competencias fiscales por otro lado van a seguir residiendo en los territorios históricos para qué hacen

en este parlamento un debate monográfico sobre fiscalidad además no se quiso durante años luchar más y mejor contra el fraude fiscal

su impacto se negó que hubiera fraude

a apelar al carácter de los vascos para negarlo o negar que fuera un problema el actual consejero de hacienda lo dijo hace aproximadamente dos o tres años y en concreto no se quiso poner en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal tal como upyd

junto con otras medidas nos habría garantizado la obtención de más recursos económicos que hubieran podido serdestinados a cubrir las necesidades reales de la sociedad vasca durante dos mil trece es cierto se ha acordado la creación de una comisión de lucha contra el fraude fiscal

de lucha contra el fraude fiscal en el seno del órgano de coordinación tributaria pero tal cosa aun siendo positiva es en nuestra opinión insuficiente y en todo caso

y se han rechazado determinadas medidas de lucha contra el fraude fiscal el gobierno vasco en concreto durante las últimas semanas ha rechazado determinadas

que upyd le propuso en el documento que hicimos entrega no voy a explicar aquí están perfectamente planteadas en esa enmienda a la totalidad propuestas novedosas para luchar más y mejor contra el fraude fiscal

qué nos dijo nos dijo que no tiene competencia normativa para establecer estas medidas concretas de lucha contra el fraude fiscal y nosotros le décimos que debería tenerlas

tenerlas pero es que además ha defendido justo lo contrario ha defendido no tenerlas y en todo caso se podría haber comprometido el gobierno vasco a plantearlas en el órgano de coordinación tributaria tal como nosotros le pedíamos en ese documento y ciertamente

no se toman por otro lado las medidas suficientes para racionalizar redimensionar o reducir drásticamente el sector público societario es decir la administración paralela es decir los centenares de opacos entes fundaciones empresas públicas y semipúblicas que siguen existiendo y por donde se nos van

los años nosotros seguimos pidiendo esa drástica reducción la consideramos absolutamente indispensable fundamental también en materia

si se acometiera este proceso tendríamos más fondos liberados o disponibles para enfrentar la crisis incentivar la actividad económica fortalecer el tejido productivo garantizar el necesario gasto social y atender a los ciudadanos están sufriendo este gobierno equivocadamente no plantea soluciones ambiciosas para resolver este grave y viejo problema

no se toman ni se plantean medidas concretas para reformar el entramado institucional vasco ni para reducir las duplicidades las ineficiencias y las desigualdades que generan no se quiso y no se quiere reformar el entramado institucional

históricos podría volver a recordar lo que habitualmente digo euskadi con sus cuatro parlamentos con sus tres diputaciones forales con sus tres haciendas con sus tres políticas fiscales que luego hay que armonizar y coordinar o con doscientos cincuenta y uno municipios el mantenimiento de todo entramado por muy histórico que sea es en nuestra opinión algo muy pernicioso para el conjunto de la sociedad consume recursos públicos que podrían destinarse a otras cuestiones más provechosas para

izateko si las reformas anteriores se hubieran llevado a cabo reforma fiscal más ambiciosa lucha más implacable contra el fraude fiscal

tendríamos más recursos para elaborar los presupuestos que los ciudadanos necesitan porque se trata de destinar los recursos públicos a lo verdaderamente

a la sanidad a la educación a la protección social al impulso de la actividad económica al fortalecimiento de nuestro tejido productivo a las becas

a ayudar a nuestras empresas y autónomos en lugar de destinarlos a mantener

o entes inútiles tampoco podemos obviar la defensa que el lehendakari ha venido haciendo durante el primer año de legislatura respecto de la necesidad de construir una nación vasca en europa ir hacia un nuevo estatus o realizar en propios años una consulta evidentemente esto

y es una razón más para votar en contra de este proyecto de presupuestos es un proyecto de presupuestos con recortes y ajustes respecto al proyecto de presupuestos

que ya rechazamos en lo que se refiere a las partidas relacionadas con la educación pública la sanidad la protección social

las becas la ciencia los centros tecnológicos y un largo

la decisión del gobierno de preferir mantener un entramado institucional poco eficiente o la pléyade de organismos públicos innecesarios que siguen existiendo antes que destinar más recursos públicos al fortalecimiento del estado del bienestar

es un grave error que perjudica a los ciudadanos además el gobierno vasco no puede excusarse como habitualmente hace en que estos son los ingresos de los que disponemos puesto que el gobierno vasco también debería poder influir en los ingresos de los que disponemos y a su vez y esto también es importante

y aquellas inversiones realmente necesarias para los ciudadanos sobre lo identitario sobre lo superfluo sobre lo innecesario o sobre lo menos

liberar los que tenemos hipotecados y priorizar correctamente el uso de los que disponemos en fin de la política fiscal ya he señalado alguna cuestión podría señalarse e insistir en la idea

y aprobada es insuficiente es poco ambiciosa

progresiva y además ha llegado tarde por un lado además de que ha llegado tarde

no ha sido lo suficientemente ambiciosa ni asegura que tengamos una fiscalidad común para el conjunto de los ciudadanos ni ha sido lo suficientemente

a las rentas del trabajo ni se han impulsado todas las reformas fiscales necesarias ni las que se han tomado han sido todo lo progresivas que deberían haber sido no se ha introducido progresividad suficiente ni en el irpf

tributen del mismo modo que las rentas del trabajo ustedes o algunos de ustedes me dirán que algo se ha avanzado y es cierto

en lo fundamental no se quiere llevar acabo el traslado de las competencias fiscales al parlamento vasco además como he señalado antes todavía no se ha puesto en marcha

de lucha contra el fraude fiscal se niega de este modo recursos económicos a la ciudadanía estas medidas deberían acompañarse

de otras medidas de otras decisiones para reducir el gasto superfluo innecesario

de modo que pudiéramos dedicar más recursos a apoyar el tejido productivo a los autónomos a las pequeñas empresas y a todos aquellos que tienen capacidad de generar riqueza y empleo se trata de destinar los recursos a lo verdaderamente importante

a financiar instituciones innecesarias o entes claramente superfluos por tanto ni se han impulsado las medidas necesarias para tener más recursos ni se han impulsado las medidas necesarias para tener más recursos liberados esto es no hipotecados ni se han elegido bien las prioridades de inversión

ni se han impulsado todas las medidas necesarias para tener más recursos ni se han impulsado todas las medidas necesarias para tener más recursos liberados ni se han elegido bien todas las prioridades de inversión y de gasto y desde luego no se han impulsado

egiterakoan en fin lo cierto es que todos los departamentos reducen sus presupuestos respecto al ejercicio dos mil doce destacan determinadas reducciones presupuestarias en determinados departamentos

lo que se refiere a educación lo que se refiere a desarrollo económico y competitividad y

disminuyen disminuyen partidas importantes de impulso de la actividad económica

de becas en fin partidas que nosotros consideramos claves para poder salir de la crisis cuanto antes se toman decisiones claramente equivocadas se prevé destinar a cooperación al desarrollo un treinta y uno por ciento menos

se mantienen las delegaciones vascas en el exterior presupuestadas en más de dos coma cinco millónes de euros y el lehendakari por cierto

fueran realmente embajadas así lo dijo y de extenderlas a otros países en un futuro próximo estas afirmaciones públicas dan cuenta de las intenciones políticas

sesenta y cinco millónes de euros se reduce hasta los treinta y siete millónes de euros se reduce

a justicia gratuita mientras se mantienen o se incrementan determinadas partidas para la euskaldunización se produce una reducción generalizada

y la competitividad el desarrollo empresarial la tecnología la investigación estratégica el turismo el comercio y la internacionalización entre otros si lo comparamos respecto a los últimos presupuesto aprobados todo esto se reduce y se reduce

es decir el gobierno no hace el suficiente esfuerzo ni todo el que podría hacer ya digo

becas innovación competitividad empredimiento internacionalización centros tecnológicos

mientras mantiene gasto innecesario superfluo o

el gobierno presupuesta para la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda una cantidad

que va a ser insuficiente y nosotros pensamos que presupuestar correctamente y ser riguroso es fundamental

va a ser insuficiente lo mismo ocurre con las ayudas de emergencia social

y otra vez volveremos a hablar el próximo año de incrementar la cuantía destinada a las ayudas de emergencia social

por muy potente que sea el sistema vasco de protección social por mucho que se quiera compararlo con lo que existe en otras comunidades autónomas españolas debe ser el último recurso

a la crisis no se acondicionan suficientemente se producen y por lo tanto lo criticamos también de manera contundente no se hace el esfuerzo necesario en los programas de becas no se hace el esfuerzo necesario en los fondos para investigación ni en lo que se refiere a infraestructuras y obras en centros educativos ni al trilingüísmo ni a la formación

fundamentales se siguen destinando ingentes cantidades de dinero público a la euskaldunización y a la normalización lingüística más de cien millónes de euros mantenido durante los últimos tiempos partidas que se mantienen siempre a pesar de la situación de crisis económica

parece preferir euskaldunizar a los ciudadanos antes que rescatarlos de la crisis y tenemos también el presupuesto de eitb que sigue siendo en nuestra opinión excesivo

respecto a los presupuestos planteados para el ejercicio dos mil trece también nos oponemos a esta medida también

el destino de los recursos públicos también nos oponemos a esta cuestión concreta eitb sí evidentemente pero replanteada racionalizada y redimensionada no se replantea no se racionaliza y no

y evidentemente eitb sí medios públicos de comunicación sí pero para que sean de verdad un servicio público no para que sea

y durante este primer año de legislatura es bastante evidente que eitb se ha convertido

por lo tanto no solamente habría que redimensionarla no solamente habría que reducir su presupuesto sino que lógicamente habría que cambiar modificar su línea editorial para que sirva a la mayoría de la sociedad vasca para que sea para que transmita las noticias tal como son no para que sea no para que siga siendo como lo ha sido hasta ahora un instrumento al servicio del nacionalismo vasco en fin estas son algunas de las cuestiones que han hecho que nosotros hayamos planteado esta enmienda a la totalidad hay más cuestiones hay más cuestiones que podríamos señalar hay un buen cúmulo de cuestiones ahí están todas nuestras enmiendas parciales planteadas

insuficientes los recursos que se destinan a la upv

etcétera ya digo no se impulsan ni se comprometen las reformas políticas que euskadi necesita ni tampoco se prioriza en nuestra opinión correctamente el gasto o la inversión y por lo tanto estas son razones suficientes razones de peso para presentar esta enmienda a la totalidad que por otro lado es coherente con otras enmiendas de que nosotros hemos planteado en el pasado en fin tenemos un problema que quizás merezca incluso una atención especial como es la deuda

millónes de euros endeudamiento bruto previsto por el

para el ejercicio dos mil catorce quinientos treinta y siete millónes de euros es lo que la administración autonómica va a tener que pagar por la amortización del endeudamiento que proviene de ejercicios anteriores lo que supone trescientos treinta y siete coma ocho millónes más que en dos mil trece en fin ahí están los gastos financieros que se van incrementando año a año ahí está la factura de la deuda que aumentará ahí está la deuda vasca que se situará al final del próximo año

ciertamente relevante que en dos mil catorce se destinará la deuda el doble que a la pobreza y evidentemente esto también nos preocupa ya digo toda esta situación no viene del cielo

situación es consecuencia de las políticas que se han venido aplicando y de las medidas que se han aplicado o que no se han aplicado en los últimos tiempos por lo tanto nuestra obligación es exigir a este gobierno desde nuestra minoría parlamentaria que impulse todo eso que nosotros venimos defendiendo en los últimos tiempos porque el gobierno no puede dedicarse únicamente

es la que es que las cosas están como están el gobierno tiene que

para eso está la política no para hacer los mismos presupuestos todos los años y quejarnos amargamente de la situación de crisis

aquello que debe cambiarse y nosotros pensamos que todo esto debe cambiarse

por lo tanto está claramente condicionado y lastrado por las reformas necesarias que no se quieren impulsar reforma del sistema tributario

lucha contra el fraude fiscal modernización

aligeramiento de la administración paralela si esto se hubiera hecho tendríamos más recursos para destinar al fortalecimiento del estado del bienestar

a la salud a la protección social a las inversiones productivas y digo inversiones realmente productivas no inversiones clientelares o inversiones

o allá en función de dónde gobierna uno u otro no inversiones realmente productivas inversiones realmente necesarias y para destinar al impulso de la actividad económica para crear empleo estable y de calidad

y tendríamos que recurrir menos al endeudamiento uno de los graves problemas que tiene a día de hoy euskadi el proyecto

la ciencia las becas los centros tecnológicos las investigaciones estratégicas etcétera etcétera este gobierno mientras reduce o no amplia suficientemente la renta de garantía de ingresos o las aes

las becas defiende sin embargo obras que no son socialmente prioritarias ni responden al interés general de los ciudadanos únicamente por acuerdos

los ámbitos de poder de cada uno y esto es algo profundamente equivocado en fin en conclusión y ya termino

que consolida recortes y ajustes que consolida un entramado institucional

y que sustenta evidentemente sustenta un proyecto político nacionalista que nosotros no compartimos en absoluto la nación vasca en europa que anunció

bultzatzen dutenak nos encontramos ante un proyecto de presupuestos continuista conservador poco ambicioso que prefiere recortar que reformar que prioriza mal y que sustenta un proyecto político nacionalista de ahí nuestra enmienda

la reforma del sistema tributario vasco y eso señor maneiro no es cierto porque reformas del sistema tributario vasco se han hecho continuamente

lo que sí es cierto es que la más profunda será la que se va a acometer este año dos mil trece la más profunda desde la aprobación del concierto económico

muchísimas ocasiones y en los tres territorios históricos también afirma usted en reiteradas ocasiones

afirmar que dicha reforma vaya a poder ser aplicada en toda la comunidad y tampoco eso es cierto porque se va a aplicar en los tres territorios aunque los procesos y los tiempos

todas las reformas van a tener efectos a partir del uno de enero del dos mil catorce

luchar durante muchos años más y mejor

no se quiso luchar y no es cierto los distintos planes de inspección de las diputaciones forales han dado en el periodo dos mil ocho dos mil doce un resultado de tres mil trescientos millónes de euros aflorados

en múltiples ocasiones le décimos que pueda y deba mejorarse el sistema pero no puede decir que no se ha luchado contra el fraude fiscal porque decir eso no es cierto es mentir

reduce su estructura institucional en un veinte por ciento

de ciento veintitrés sociedades participadas a ochenta y seis de una estructura directiva de doscientos treinta y nueve personas a ciento noventa y dos

en el proyecto de dos mil catorce la reducción total de altos cargos y personal eventual es de cincuenta y siete personas de doscientos setenta y ocho se ha pasado a doscientos veintiuno reduciendo la estructura en un veinte coma cinco por ciento y el presupuesto correspondiente en tres siete millónes de euros bestalde

debería haber procedido a enmendar el articulado del proyecto de ley de presupuestos incluyendo una nueva disposición derogatoria

entidades pero debo decirle que dichas entidades han sido creadas porque esa ha sido la voluntad de este parlamento vasco y así

resulta necesario analizar la ejecución presupuestaria en esta materia y la evolución es la siguiente la ejecución del dos mil doce fue de doce millónes ochocientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres euros la ejecución del dos mil trece

el porcentaje de variación fue ha sido una reducción

y de estos datos se concluye que desde el ejercicio dos mil doce al dos mil trece hay una inflexión a la baja en la demanda de esta prestación y que los doce

suponen un incremento global del once coma sesenta y seis por ciento del total de las cuantías dedicadas a financiar esta actividad

la demanda que se pueda presentar epaitegietako langileen euskalduntzea aipatu izan duzu y en lo que se refiere a la argumentación que se realiza citando lo que se destina a la euskaldunización de la administración de justicia comparándola con una supuesta

a la financiación de la justicia gratuita los datos ahora expuestos vienen a desmentir ese argumento

pero el gobierno ha manifestado reiteradamente en reiteradas ocasiones en sede parlamentaria en esta cámara que recuperará

las magnitudes presupuestarias manejadas para la cooperación para el desarrollo en ejercicios precedentes sin renunciar a avanzar en el compromiso de alcanzar el cero coma siete por ciento del presupuesto disponible

handiagoak el departamento de desarrollo económico y competitividad con cuatrocientos dieciséis millónes de euros es lo suficientemente importante

poner todos los recursos necesarios para gestionarlo de una manera eficaz este presupuesto el presupuesto de este departamento tiene tres características se sigue priorizando la industria se mantiene una acción de gobierno e interdepartamental conjunta y coordinada

en definitiva atendiendo a la realidad y dificultades económicas del momento sigue reforzando el esfuerzo en política industrial sosteniendo la innovación y le añade un esfuerzo crediticio

mediante una priorización adecuada del destino de los presupuestos y mediante el uso eficiente de los recursos disponibles así en el presupuesto del dos mil catorce se vuelve a asegurar el gasto correspondiente al principal de los recursos de educación del sistema el profesorado además está previsto aumentar en más de ciento treinta millónes de euros el presupuesto del conjunto del departamento para poder incidir en materias educativas que

el gobierno ha podido comprobar que necesitan de una mayor cobertura así como en becas en transporte del alumnado con necesidades educativas especiales

gehiegizko finantziazioa daukagula que estamos sobrefinanciados

es y será lograr el máximo bienestar para la ciudadanía vasca y lograr

la máxima estabilidad institucional posible con la aprobación de los presupuestos que el gobierno ha presentado en esta cámara se lograrán ambos objetivos bienestar para toda la ciudadanía vasca y estabilidad